hauen ordezkariak herri ordezkariak eta erakundeak la casa de la palabra la casa de todos y todas las ciudadanas puertas abiertas participación muchas veces se nos llena la boca con estos conceptos

demos la palabra a los agentes educativos trabajemos todos juntos para decir

quién se puede negar a ello ulertezina da pnv

a euskadi en el pelotón de los más torpes de europa algo que el ejecutivo no va a permitir porque nos jugamos el futuro de euskadi no nos estamos jugando ese futuro la educación no es una clave fundamental para la formación integral de las personas y para la supervivencia del pueblo vasco

hasiko naiz señora celaá vamos a intentar situarnos en la realidad porque una cosa es estar en las nubes

no tiene más que mirar justo a su derecha aquí a mi izquierda y este pueblo quiere no depender de madrid quiere hacer su propio camino es así de sencillo ya sé que esto no le gusta no sé quién está más en las nubes por lo tanto pero vengamos

rajoy recomendó en septiembre de dos mil ocho la objeción de conciencia por una asignatura la de la ciudadanía ahora es por una ley la educación no se impone la respuesta en este caso es objeción de conciencia orain dela egun batzuk esan zuen

para proteger nuestro sistema educativo gu prest gaude horretarako ez izan zalantzarik porque no es nuestra

se trata del futuro de nuestra educación y de nuestro pueblo de eso estamos hablando no confunda los términos señor oyarzabal beraz ez dugu ulertzen

en eso coincidimos y el pnv quiere una educación consensuada con la comunidad educativa en eso también coincidimos que busquemos el consenso con la comunidad educativa

y con los agentes políticos también que eso es lo que pretende la ponencia y eso es lo que está planteando euskal herria bildu cuando plantea la ponencia eso mismo que usted ha dicho esta mañana por lo tanto no entendemos la postura del partido nacionalista vasco

egon badago porque qué les van a decir a los agentes educativos cómo van a justificar ustedes que no

por qué les quieren negar el diálogo en esta cámara en esta cámara que es la casa de todos la casa de la palabra puertas abiertas participación por qué

ponencias creadas sobre todo para eso para facilitar que todos hablemos y que todos nos pongamos de acuerdo

bertan esaten du el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que todos los pasos que sean necesarios para promover un amplio consenso en el ámbito educativo especialmente y en el ámbito social y político entorno a una ley vasca de educación guk erdibidekoa proposatu dizugu ezetza jaso dugu

creará una ponencia para esto para llegar a una ley vasca porque nosotros estamos de acuerdo con la ley vasca hori behin baino gehiagotan

puntu bat esaten genuen así como debatir y acordar mecanismos para hacer frente

arratsalde on guztioi señor agirrezabala acaso pone usted en cuestión

defendiera la educación vasca acaso la pone usted en cuestión

que usted mantenga y sostenga ante esta cámara una posición tan reduccionista tan primaria como la de afirmar que efectivamente por una parte está la euskal herria de ustedes se entiende

la españa del grupo popular y del grupo socialista con todos los respetos señor he de decirle que esa es una posición absolutamente simplista absolutamente reduccionista

hoy qué es euskal herria euskal herria es el territorio de la lengua y la cultura vasca

ese espacio común en lengua y cultura vasca que compartimos efectivamente con navarra y con el país vasco francés eso es euskal herria hoy

que es el pueblo vasco y euskal herria se constituyen la comunidad autónoma vasca

por lo tanto si queremos hablar de la realidad hablemos desde la realidad

según todas las anotaciones solo el veinticinco por ciento de los vascos parece inclinarse por la independencia mientras el veintinueve por ciento no lo hace y el resto ya veremos si llegara pero es que

y ya veremos cómo se desenvuelve el asunto

es que a día de hoy los estados los países las constituciones

son federales y esos son los países que han venido progresando durante años entendiéndose resolviendo sus diferencias sus discrepancias

esos son por tanto claridad claridad por favor

de un manotazo simplemente a grupo popular grupo socialista banco en españa y nosotros aquí en euskal herria acompañados de

eso no es así por tanto nosotros hemos defendido y hemos presentado treinta y seis propuestas de resolución defendiendo las competencias

que las tiene pero no todas lógicamente

como tampoco las tiene por tanto esas son las treinta y seis propuestas de resolución que hemos presentado y sí nos sorprende que ustedes solo hayan presentado una porque es verdad que ya

por cierto como el resto de agentes educativos no todos

no se puede hablar en nombre de todos oiga entonces no todos

los agentes educativos y sociales la mayoría

ya lo hemos anotado pero usted ahora solo quiere una ponencia cual si fuera el bálsamo de fierabrás es decir vamos todos a la ponencia a decir lo que pensamos de la lomce pero si llevamos un año

todos entonces usted dígame cómo va a gestionar usted levanta unas expectativas

tiene que gestionar la frustración qué frustración pues la frustración de que si esas fuerzas que usted adivina van a congregarse

quién gestiona esa frustración que este gobierno no va a hacer se lo garantizo pero ni si usted estuviera en un gobierno tampoco lo haría se lo garantizo también

también los he visto tampoco lo haría por qué no lo haría

y desde luego cuando uno tiene que dar un título de la eso y un título de bachiller

con qué la titulamos qué hacemos si ustedes alguna vez consiguen esa pretendida independencia que dicen ustedes van a poder lograr porque están en esa euskal herria que ustedes todavía no están pero dicen que están entonces entonces

es hoy y hoy por hoy desde luego no solo este país sino el resto de países y los sondeos que

por tanto claridad y por tanto realismo sí que he decir que francamente las enmiendas pasadas por el partido popular me han producido una sorpresa inmensa una sorpresa inmensa porque claro yo ya sabía que al señor oyarzabal no le gustaba la lomce

porque sí le hubiera gusta la lomce al señor oyarzabal me hubiera apoyado multitud

que hacemos aquí que las ha venido apoyando porque claro las propuestas de resolución que nos plantea el grupo popular que son doce pues de ellas francamente

el aprendizaje del inglés impulsar la formación profesional dual que hacemos máxima calidad debe ser un objetivo prioritario mejorar los resultados del sistema potenciar las tecnologías de la información y la comunicación fortalecer la figura del profesorado defender la libertad educativa atención a la diversidad la inclusividad la equidad la igualdad de oportunidades vamos que esto no es la lomce

esta mañana yo he pretendido sin éxito por lo que veo llevar a su ánimo que eso no era la

por tanto nos hemos equivocado de debate porque ha multitud de propuestas como estas que usted pusiera a lo que significa la mejora de nuestro sistema educativo pues para dos lo que pasa es que esto no es la lomce este es el problema entonces

qué pasa con algunas de las propuestas que nosotros hemos planteado pues mire nosotros las propuestas que hemos transado como aproximadamente no se si llega a la mitad pero la mitad con el grupo nacionalistas vascos van fundamentalmente orientadas a lo siguiente orientadas a la defensa de nuestras competencias

a procurar no hacer nada que no tengamos que hacer obligatoriamente a tomar nuestro tiempo a exigir nuestro tiempo para desarrollar nuestras competencias porque es muy difícil llegar al catorce quince con la introducción de primaria

muy difícil a presentar los recursos en el marco de la ley a pedir suspensiones cautelares en el marco de la ley es decir a defender nuestro sistema educativo con respecto a la lomce y eso es lo que pretendemos hacer a qué más

ciertamente tratar de defender lo que significa el impulso de modernización del sistema educativo vasco porque tenemos que enfrentarnos a los desafíos globales no podemos perder el tiempo como estamos perdiendo el tiempo llevando mas de un año y pico hablando de la lomce y entonces hay que

cuales son esos desafíos en este mundo global y algunos hemos empezado a trabajar y son las tecnologías de la comunicación

trilingüismo que en el último sociómentro vasco aparece respaldado por un cuarenta por ciento de familias frente a un treinta por ciento que respalda el modelo quinientos y esto también es realidad

entonces qué ocurre que la inmensa mayoría de las familias vascas cuestionadas quieren un modelo trilingüe es decir nada de modelos lingüísticos ni a

y trilingüe quiere decir no solo enseñar ingles sino enseñar en ingles para que no haya una generación como la

de personas que para aprender una lengua extranjera han tenido que tener dinero

esta es la realidad por lo tanto queremos igualdad de oportunidades igualdad igualdad de oportunidades

otra cuestión que hace y que hacen nuestras propuestas es vigilar muy atentamente para que nuestra política no se separe

es decir so pretexto de pretendidos epígrafes hechos en negrilla no hay

el sistema educativo español es el más eficiente que hay a juzgar por los escasos recursos económicos que toma para llegar a determinados resultados o sea que cuando ustedes hagan la comparativa pongan en la coctelera también que el gasto o la inversión en educación con respecto al pib ha bajado un tres coma ocho bien y la siguiente pues es efectivamente que queremos una escuela pública ahora

pero conocemos las características del sistema educativo vasco la oferta complementaria entre la red concertada y la red pública y la hemos venido respetando porque la aportación que hace la red concertada

un gobierno vasco su primera obligación es tener como referente siempre a la educación pública siempre más allá de que obviamente observe atienda respete y además

y hemos querido y queremos también extender nuestras ideas hasta lo que significa una escuela laica

propia de un estado aconfesional laica es decir que no décimos que la religión sea expulsada de la escuela decimos que esté fuera del currículum educativo

y espacios para la religión pero lo que no podemos tolerar es uno

por convenio no solamente tengamos religión sino que además los alumnos que elijan religión

a otros a que obligatoriamente tengan que tener una alternativa evaluable

o para ir a la universidad esto es verdaderamente inaceptable

claro que no no lo hicimos pero tampoco la jerarquía eclesiástica había llegado al punto que ha llegado es decir y se lo digo además esto también es objetivable oiga mire usted por eso decía yo también lo del papa francisco

mire usted la religión para que usted sepa la religión no estaba como una asignatura espejo eso no es verdad

simplemente se compaginaba con un estudio asistido y con nada en el bachillerato la señora uriarte ha tenido la buena idea de ponerle una asignatura espejo en el bachillerato ahora a la religión pero eso no estaba en la loe eso no estaba en la loe y yo

del tribunal era muy diferente sin embargo así lo han interpretado los servicios que le han atendido jurídicos a

que era posible también por tanto lo que quiero decir es que la escuela la educación

es laicidad es decir la laicidad no es contraria

justamente lo contrario y la escuela tiene que mantener un sistema educativo libre de confesiones religiosas un currículo libre de confesiones religiosas y las confesiones religiosas pueden alojarse en la escuela pero desde luego no dentro del currículo y mucho menos ser evaluables esto es una cuestión grave

que le pongan una alternativa a poder ser lo más fuerte posible en el lado contrario eso es lo que ha pretendido siempre

eso es tener la religión blindada oiga ya sabe usted lo que le digo perfectamente por tanto

nosotros pensamos que el debate es útil pero ciertamente no nos podemos agotar en nuestra propia salsa por tanto

generaría una frustración importante no se trata de no ir la comisión de educación está abierta

y a todas las instituciones que quieran venir a decirnos a pedir a ser oídas pero considero que realmente

la ponencia lo que sí resuelve nuestros problemas es tener mucha claridad

y desde luego no permitir de ninguna de las maneras que siga continuándose sin progreso es preciso poner el progreso por encima de todo porque las generaciones que están en este momento educándose esas no se repiten tienen las oportunidades que tienen y no podemos vulnerarlas

presidenta buenas tardes a todas y a todos de manera breve básicamente para enumerar las once propuestas de resolución que hemos presentado porque

a lo largo de la mañana ya hemos expuesto cuál es nuestra posición contraria

cuáles son las razones por las cuales nuestra posición es contraria

y cuáles son las razones también por las que defendemos la necesidad de aprobar una nueva ley de educación nacional que sustituya a la actual para resolver los problemas existentes en el sistema educativo español es decir que no pensamos que baste como algunos grupos plantean

a la situación anterior sino que lo que nosotros defendemos es la modificación de la actual ley para ya digo resolver los graves problemas que sigue teniendo y que ha padecido a lo largo de los últimos años el sistema educativo español

de resolución en la primera de ellas mostramos nuestro rechazo

en la línea de los argumentos explicados tanto aquí en este parlamento como en el congreso de los diputados proponemos que este parlamento rechace la lomce y explique por qué lo hace en concreto porque no sirve para resolver los problemas de la educación como el fracaso escolar el abandono temprano y el bajo nivel de conocimientos y porque mantiene la existencia de diecisiete subsistemas educativos ignora el problema esencial de la selección y formación del profesorado y su movilidad profesional y geográfica reduce la autonomía de los centros renuncia a la ampliación de la red pública e introduce un favoritismo descarado hacia los centros privados concertados entre otras muchas razones que he explicado

decisiones concretas que nosotros consideramos un despropósito en concreto proponemos que este parlamento rechace la introducción de la

ya que el currículum no debe contener asignaturas confesionales ni contenidos orientados

religioso ideológico o identitario proponemos también que este parlamento rechace que se devalúe la formación profesional

categoría y que se postergue como alternativa prestigiosa

el bachiller con la propuesta de resolución número cuatro proponemos que este parlamento rechace que se dé carta de naturaleza a la educación segregada por sexos sistema que contradice el principio de coeducación y que no debe ser admitida en el régimen de conciertos al tratarse de una

que modifica de manera sustancial el proyecto educativo público y la propuesta

para que este parlamento rechace la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía asignatura que nosotros siempre hemos considerado fundamental para asentar una formación en valores en el alumnado a partir de la propuesta de resolución número seis realizamos una serie de peticiones y exigencias

estos meses atrás en el congreso de los diputados proponemos instar

a impulsar un currículum integrador y laico preocupado por la educación en valores con asignaturas orientadas al cumplimiento del precepto constitucional según el cual la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales con la propuesta número siete de resolución

al gobierno de españa a impulsar una nueva ley de educación que busque el mayor consenso posible con vocación de perdurabilidad cosa que esta no tiene

una ley que fomente un sistema educativo coherente y que garantice una formación de los alumnos basada en principios éticos y políticos comunes

religiosas o ideologías con la propuesta de resolución número ocho proponemos instar al gobierno de españa a impulsar una nueva ley de educación que aspire

eliminando las barreras territoriales de acceso y facilitando la movilidad del profesorado y del alumnado por todo el territorio nacional con las propuestas número nueve y diez planteemos una serie de exigencias

instar al gobierno a impulsar un trabajo decidido para disminuir la tasa de abandono educativo temprano mejorar el nivel de conocimientos en materias prioritarias incrementar la autonomía de los centros docentes mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras

personal de nuestros jóvenes y finalmente con la propuesta de resolución número diez proponemos instar al gobierno a evitar cualquier propósito de adoctrinamiento ideológico e imposición de los postulados ideario e imaginario nacionalista bien a través de la aprobación de un nuevo currículum

o bien a través de cualquier otra medida algo que históricamente el nacionalismo vasco ha llevado acabo y finalmente lo que proponemos con esta

es defender un sistema educativo progresista laico y de calidad

el desarrollo de la red pública como columna vertebral del sistema en fin nosotros hemos tratado de recoger en estas once propuestas de resolución no todo lo que consideramos necesario en relación a este asunto pero sí

consideramos fundamentales respecto a las propuestas de resolución del resto de grupos votaremos a favor de aquellas que recojan

votaremos en contra de la ponencia que propone eh bildu no vamos a votar a favor de la derogación de la ley para volver sin más

ya hemos dicho que es necesaria una nueva ley de educación y que por lo tanto

hay que resolver los problemas actuales y para eso hace falta una modificación de la ley actual hacía falta una modificación de la ley anterior y visto

de esta ley también que entra ahora en vigor habrá y hay propuestas de resolución hay bastantes propuestas de resolución

nosotros mostramos nuestro rechazo a la lomce en todo caso compartiendo el rechazo

solo votaremos a favor de aquellas propuestas de resolución que contengan las razones por las cuales razones por las cuales nosotros rechazamos la lomce es decir no por cualquier otra cuestión

que votaremos a favor de algunas de las propuestas de resolución planteadas por los distintos grupos nada más y gracias eskerrik asko

muchas gracias presidenta señorías lehendakari bien pues

y sinceramente he leído con mucho cariño las propuestas que han presentado ustedes es verdad que

y también una propuesta que le he escuchado al señor maneiro para ver si le apetece

de la octava propuesta de resolución de upyd pero señorías hablando en serio treinta años de leyes socialistas

treinta años con el mismo sistema diseñado por el partido socialista diferentes leyes porque ellos se van auto enmendando

de leyes de educación socialistas hoy incapaces en españa de reconocer deficiencias de reconocer desequilibrios de proponer modificaciones de calado y nosotros desde el partido popular

a ver si en este intento ya

de dar una oportunidad al cambio y de defender aquí una oportunidad para el cambio en la educación en españa

la educación ha sido un factor tan decisivo no solo para la realización personal de cada individuo como decía por la mañana sino también

para alcanzar mayores cotas de progreso social y económico hemos perdido a nuestro juicio demasiado tiempo la última década especialmente ha sido todo un lío de debates educativos que al final no se han traducido en ninguna seria de mejora que nos acerque a los países de nuestro entorno y creemos que no se puede cometer ni un error más no podemos desaprovechar esta oportunidad desde luego nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para el sistema educativo español para los profesores a los que se les ha negado sistemáticamente la posibilidad de desarrollar sus capacidades en estos años y se les ha hurtado la autoridad

a las que permanentemente se les cuestiona el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos se les cuestiona también el derecho a

que para nosotros para el partido popular constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo constitucional y esa libertad de enseñanza es la que queremos defender a través de esta ley

se mueve a mi juicio en un desesperante conformismo que oculta desde luego una capacidad

ellos están enrocados este es este modelo da igual que este modelo

de cada cuatro alumnos nos da lo mismo que este

el país con mayor desequilibrio en los resultados entre regiones entre comunidades autónomas les da lo mismo ellos creen

y desde luego los que les facilitan muchas veces esas leyes

solo ellos están legitimados para decir cómo de qué forma y quién y para quién tiene que ser la educación en españa

de quienes se creen los únicos capacitados para hablar para tomar decisiones y para aplicar leyes de educación en este país no puede ser y por eso creemos que este país se merece una nueva oportunidad después de treinta años oiga algún retoque vamos a hacer algún retoque a ver si podemos

a cualquier tipo de reforma pero nosotros estamos empeñados en emprender una serie de reformas que nuestro país necesita algunos lo he dicho esta mañana se empeñan en confundir igualdad de oportunidades con igualdad de resultados y confundir

es un error a eso no se le llama equidad y mucho menos cuando la igualdad de resultados es por abajo por abajo como demuestran los resultados educativos en españa si los comparamos con los países de nuestro entorno

les asusta la evaluación de resultados no sabemos exactamente por qué esos miedos si tan orgullosos estamos de nuestro sistema educativo también en el país vasco qué miedo hay a la evaluación

en estos años evaluación transparencia autonomía y rendición de cuentas son exactamente

han mejorado de manera más notable sus resultados en educación por eso nosotros sin tratar de reproducir debates de esta mañana

trasladarle también otro mensaje al ministro wert que las llamadas al diálogo las llamadas a volver a sentarse

a decirle bueno vamos a ver cómo aplicamos esto vamos a esperar un poco son

esta mañana estrategias dilatorias para tratar de impedir

se ponga en marcha y se aplique y a ver si el partido popular

si conseguimos poner trabas en el camino hacer perder el tiempo tres años al gobierno en aras al diálogo en aras al consenso hoy aquí

que van a utilizar todas las posibilidades que tengan en su mano

luego las llamadas al acuerdo las llamadas al consenso las llamadas a una aplicación pausada

no son más que una treta para tratar de evitar la aplicación de esta desde luego nosotros trasladaremos ese mensaje también con todo el cariño pero desde luego con un mensaje también muy claro nosotros tenemos que ejercer nuestra responsabilidad

con una mayoría de españoles detrás que nos ha elegido para tomar determinaciones y para tomar decisiones y para emprender reformas aquellas reformas que creemos de verdad que son necesarias para mejorar la educación en este país y tenemos que llevar adelante esa reforma la vamos a llevar adelante

por supuesto que sí doce propuestas de resolución que por supuesto que señora celaá usted las podría votar todas las doce y seguramente la mayoría de los grupos de esta cámara porque estamos planteando como propuestas de resolución cosas muy sensatas

más allá de la demagogia de los titulares de las frases gruesas y de las falsedades

que a base de repetirlas puede que en algunos sectores hayan ido calando

muy sensatas dice cosas que todos compartimos y que todos podríamos votar aquí y si le parece que estas cosas que propone el partido popular no son la lomce vótelas no tenemos ningún inconveniente en que se voten estas cosas

en que se vote a favor de evaluar en que se vote a favor de la calidad a favor de la formación profesional a favor de una educación inclusiva claro que sí queremos que ustedes voten

a favor de la apuesta por el inglés claro que sí a favor de las nuevas tecnologías

de la educación en españa y a favor de la coherencia de nuestro sistema educativo y a mí escucharle las cosas que le escucho a la señora arrondo y a los representantes de bildu en educación pues ya

ellos por supuesto que están en contra de la lomce y después de las burradas que dicen es que hasta me chocaría que estuviesen a favor

en contra de todo lo que va a favor de españa ellos se oponen a todo lo que consideran que puede mejorar algo

es algo fundamental para españa y por supuesto que mejorar la educación de nuestro país es algo fundamental

lo que yo lamento lo que a mí me entristece es que el partido socialista

se una a esos se una a los que se empeñan en mantener las diferencias se empeñan en mantener la desigualdad de oportunidades en españa se una a los que se empeñan en decir que esta ley es una ley

se une a ese discurso el partido socialista debería estar defendiendo la coherencia del sistema educativo en españa el partido socialista no debería defender diecisiete

no debería defender el partido socialista perpetuar consolidar las diferencias estructurales entre el sistema educativo en el país vasco y el de andalucía

muchas responsabilidades perpetuar las diferencias en españa eso es lo que quiere hacer el partido socialista de euskadi

no defender la coherencia no defender un sistema educativo para españa

ofiziala den beste hizkuntzan ezarritako ezagutza eta erabilera helburuen arabera en virtud de lo dispuesto en el artículo tres de la constitución

asimismo de la disposición adicional primera de la constitución se entenderá que la regulación del uso de las lenguas en el sistema educativo vasco

al objeto de preservar el carácter singular de la formación lingüística corresponde a la comunidad autónoma de euskadi el desarrollo de la regulación del currículo de las lenguas oficiales que comprende la determinación de las enseñanzas mínimas en relación

como conocimiento y uso de las dos lenguas cooficiales de castellano y euskera en el marco de los diferentes principios básicos del sistema educativo vasco

no compartimos que los consejos escolares pierdan la condición de órganos de gobierno o con capacidad de decisión para convertirse en órganos consultivos y de asesoramiento asimismo apostamos por la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa así pues instamos al gobierno vasco a continuar defendiendo el autogobierno de euskadi la calidad de nuestro sistema educativo y los derechos lingüísticos y educativos de la ciudadanía vasca

de presentar recursos en los tribunales en defensa del autogobierno vasco bikaintasunaren inguruan eusko jaurlaritzari eskatzen diogu

eskerrik asko mahaiburu andrea señora celaá he llegado a pensar que usted era la consejera en este gobierno también cuando me dice que este gobierno no va a ir a la insumisión no sé si

no le han avisado los suyos que ya no está en el gobierno parece ser que no no sé si lo comentaron una noche y todavía no le han avisado los suyos que no están en el gobierno porque me ha dicho que no que este gobierno que de ninguna de las maneras

va a hacer planto ni va a ser insumiso con respecto a la ley

la señora celaá todavía sigue de consejera no vamos un poco ya

me dice a mí que nosotros tenemos una posición reduccionista primaria simple

señora celaá y luego me empieza a hablar de federalismo y no sé qué más cuestiones a ver lo que sí le quiero dejar

a dónde queremos ir y aquí hay una lengua aquí hay una cultura y aquí hay un deseo un deseo

cómo lo sabe si apenas nos dejan decidir si no nos reconocen ni el derecho a decidir cómo lo sabe usted pero yendo a lo que estamos en este momento

hay que ser realistas y que usted es la realista y nosotros

pues mire usted el realismo que usted está planteando es la aplicación de la ley

en sus propuestas de resolución es decir instar o ir al tribunal constitucional a decirle cuáles son los artículos que

toda la ley pero déjeme que le diga que en este caso

no queremos aplicar la ley y eso es lo que estamos diciendo cuando planteamos la ponencia porque realmente le tengo que decir que me he quedado bastante preocupado cuando usted dice que la ponencia genera mucha frustración

a los que estén en la ponencia del amianto que esa ponencia no vale para nada

eso les está diciendo ese es el mensaje que está transmitiendo o a los que están trabajando el cannabis o a los que hace quince días estuvieron aquí no sé por qué se ríen digo porque hace quince días se aprobó con los votos del partido nacionalista vasco una ponencia acerca de la juventud para hablar de los problemas

que hay que dar a la juventud estos días es que no sé por qué le tienen miedo a la ponencia que no señora celaá

que no va a generar frustración porque

los agentes educativos es que sentándose hablando metiendo horas es posible llegar a acuerdos eso es lo que posibilita una ponencia eso es lo que posibilita un grupo de trabajo como estamos planteando nosotros aquí

fíjese si va de las palabras a los hechos por lo menos estamos planteando una ponencia donde podemos sentarnos y hablar tranquilamente y meter las horas ese foro

de algunas también se han ido pero han votado ponencias por lo tanto eso es de lo que estamos hablando de una propuesta realista

los agentes educativos que han llegado a acuerdos hay unos acuerdos tomados ya hay un recorrido hecho podemos partir sin ningún problema de ahí eta pnvri dagokionez akzio zehatzak ez dakit

es que y tú más por que me dice la señora arrizabalaga esaten dit ez ez guk hogeita hamairu presentatu ditugu eta zuek bat o sea que es cuestión de presentar cien ciento cincuenta se trata de eso

jadaa ateratzen baldin bazara no me extraña

cómo algún retoque es un cambio de filosofía total absoluta entero entero no es una cuestión de corregir errores los cincuenta y siete artículos

tiene usted algún error conceptual mire usted cuando hablamos de igualdad no estamos hablando de igualdad de resultados sino de igualdad en el acceso de igualdad de posibilidades de igualdad de oportunidades de la aristotélica no no no

nada sería mejor que decir oiga vamos a poner el sistema educativo vasco los resultados del sistema educativo vasco en extremadura no sería posible porque mire

legislación orgánica básica que ha podido producir no solo en el sistema educativo vasco sino en algunas otras comunidades resultados tales como no llega al doce por ciento el índice de abandono escolar temprano tenemos más de un ochenta por ciento de bachilleres tenemos un índice de escolarización infantil altísimo etcétera es decir equivalente al europeo

pero qué pasa pues que no solamente son los sistemas educativos sino son los sistemas sociales la cultura

el sistema productivo tiene una incidencia capital el sistema productivo tiene una incidencia capital

ha habido conexión cultura escuela empresa durante muchísimos años y eso realmente nos ha permitido tener una fp floreciente una fp dual

pero no podemos confundir lo que es la igualdad en el acceso con la igualdad de los resultados porque lo propio de la educación es el valor añadido ese es el problema de la lomce precisamente y usted lo ha dicho es decir cuando dice es que hay que buscar la igualdad de resultados es que no puede haber

añadido usted no me puede comparar un centro educativo un instituto un lo que quiera de un lugar que va atendiendo a personas socialmente desfavorecidas con los resultados de otro que sencillamente acoge niños que hacen casi la carrera en el comedor de su casa no me lo puede comparar y ese es el problema nada de lo que nace heterogéneo puede ser equiparado en resultados por lo tanto lo importante de la educación es el valor añadido eso es lo que hay que medir y esto que dice que qué miedo tenemos para las evaluaciones pero si las evaluaciones están aquí

primero cada año y luego cada dos años ahora y todos los resultados se hablan con la comunidad educativa para el proyecto de centro y todos los resultados se hablan con las familias

eso es lo que no queremos no queremos porque eso no mide el valor añadido

una intensidad en la demanda para algunos determinados centros con lo cual otros y otros padres y otros niños quedarán desfavorecidos porque no podrán entrar

el problema es que ustedes no son capaces de considerar que ese veinticinco por ciento que ustedes dicen ahora que realmente se da en abandono escolar temprano era la misma cifra que en el año mil novecientos setenta y cinco por ejemplo podría acceder eventualmente a entrar a la universidad

camino de sancho panza y don quijote porque fíjese usted en el año mil novecientos noventa y ocho las personas con estudios primarios el índice

y con esa legislación que usted denosta tanto socialista

menos con ustedes se ha podido pasar a recortar un dieciocho por ciento menos en lo que significa ese índice estando en un cuarenta y nueve por ciento y qué decirle de la fp superior y universitaria que se han aumentado diez puntos

realmente las leyes socialistas han tenido la superioridad de que han podido ser acordadas

hubiera habido una modulación menos frecuente pero

consejera yo creo que si usted que no ha escuchado esta mañana

habría visto que efectivamente el gobierno vasco dice que no puede correr riesgos con el tema de la titulación y por lo tanto que

considerado parte del gobierno pero lo que sí usted se ha considerado es la voz del pueblo esa sí porque usted ha dicho que tenían una lengua una cultura y un deseo nosotros tenemos la misma lengua las mismas lenguas

y muchos deseos pero yo le digo que cuando vayamos a la liza

o se pregunta porque cada vez que se pregunta ocurre serán muchos más los ciudadanos y las ciudadanas

evolucionar con el resto y la mayoría de la sociedad vasca y desde luego no derivándose por la separación sino más bien por la conjunción de los deseos

la integración la conjunción y no la separación eskerrik asko celaá andrea euskal talde popularraren

muchas gracias y brevemente para explicar que nosotros votaremos a favor

contra el abandono educativo temprano y la que plantea políticas contrarias

íbamos a votar a favor de unas cuantas más del partido nacionalista vasco pero realmente se ha puesto a transaccionar con el partido socialista y las ha estropeado entonces nos vamos a quedar en apoyarle solo tres la veinticuatro

y la treinta y dos que trata de actualizar y mejorar el sistema educativo vasco de acuerdo también con los agentes sociales yo me quiero referir especialmente a una de las cuestiones más recurrentes sobre las que se ha discutido en el país vasco y es

ataca el euskera además de atacar nuestras competencias

el gobierno vasco se lo ha reprochado muchas veces la señora celaá ha mantenido un perfil bajo porque el pnv y el gobierno vasco saben que esta ley no es tan mala como aparentan decir

si tuvieran que pagar el recurso ante el constitucional de su bolsillo a qué no lo presentaban porque saben perfectamente que esta ley es perfectamente constitucional lo que pasa que bueno

el recurso al constitucional pues toma y si hay tres como lo pagamos todos el problema es que lo pagamos todos y si de paso tratamos de retrasar un poco la historia

esta ley respeta mucho más las competencias lingüísticas de las comunidades autónomas que lo que teníamos antes vamos a ver el establecimiento del curriculum de la asignatura de la lengua cooficial de las comunidades autónomas a ver si nos leemos la ley o igual no sé en qué borrador estaban

se reserva íntegramente a las comunidades autónomas aquí wert aunque tuviese alguna intención no va a poder meter mano entonces se reserva íntegramente a las comunidades autónomas

es el que determina el currículo en su integridad los objetivos los horarios los criterios de evaluación la metodología todo lo va a decidir el gobierno vasco en la materia

que se denominan troncales en al menos un cincuenta por ciento su curriculum el diseño la definición de los contenidos

se lo reserva el estado por supuesto que en la responsabilidad que le compete

en las materias troncales y entonces ha decidido las lenguas cooficiales las separamos las vamos a incorporar al bloque

configuración autonómica precisamente en ese bloque para que las competencias sean de las comunidades autónomas y puedan operar plenamente en materia lingüística pues no

han decidido que sacarlas del bloque de troncales es hacerle un feo tremebundo y están poniendo al pairo a la lomce diciendo que esta lomce invade competencias y que va contra el euskera

ministro le van a poner a parir igual van a decir que te metes sácala de ahí

que el gobierno de españa decida sobre el cincuenta por ciento de la asignatura que parece que están pidiendo desde el país vasco porque están muy ofendidos

y nos ocupamos de opinar pero no ha decidido que sea todo

a planificar por el gobierno vasco y también nos quejamos es que es que es tratar de engañar a la gente de una manera permanente de una manera permanente

con las competencias vamos a ver el estado hace uso de las únicas muy pocas competencias que les reserva la constitución y es la homologación de títulos y es la evaluación

porque las leyes socialistas también reservaban al estado definición de contenidos en el curriculum claro

qué ha hecho el gobierno vasco durante todos estos años pasarse por el arco del triunfo las enseñanzas comunes

no han cumplido sus obligaciones el gobierno vasco en materia educativa durante muchos años ha actuado con una enorme deslealtad incumpliendo la ley y el estado ha dicho voy a ejercer mis competencias y entonces por supuesto que ahora solo vamos a definir los contenidos en unas asignaturas no en todas como antes total no lo cumplen solo en unas eso sí vamos a poner una prueba de evaluación en toda españa y a cada comunidad autónoma se le va a plantear un examen nacional

y eso es lo que aquí ha puesto nervioso a todo el mundo porque tenemos miedo tenemos miedo a que nos examinen a la evaluación externa a que corrijan a nuestros alumnos en vez de hacer nosotros el examen definir el examen y corregirlo nosotros mismos

tenemos miedo a la evaluación externa no estamos tan orgullosos de nuestro sistema educativo

nosotros somos los primeros que tendríamos que estar de acuerdo con la rendición de cuentas claro que sí y con la evaluación de resultados para demostrar si es cierto que estamos por delante

sabes por qué saben por qué porque aquí lo que hay miedo es a que

obliguen al gobierno vasco a cumplir la ley de una vez por todas de una vez a cumplir la ley que es lo que no se ha cumplido durante tantos años lo demás es demagogia falsedad y tratar de buscar la bronca

sin ningún tipo de razón porque esta ley lo que viene efectivamente es a corregir y a yo

señora presidenta algunos creen que esta ley desde luego no llegará a entrar en vigor porque están ya contando los minutos para que el partido popular

que se junten ya unas cuantas tardes que empiecen ya que empiecen a juntarse

porque sus discursos son absolutamente contradictorios poner de acuerdo

en un documento alternativo les va a llevar un rato yo les aconsejo que empiecen ya a juntarse por las tardes para preparar una ley alternativa para cuando el partido popular

que no hay ni coherencia ni criterio en lo
que ustedes están planteando si lo quieren reunir en un documento propio nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna amaitzeko

suelen decir que quien no tiene respuestas concretas solicita la creación

emango zergatik en cuanto a la calidad de la educación entendemos que afecta a todo el sistema educativo

la educación pública en euskadi es solo del cincuenta por ciento el sistema tiene que tener como centro el alumnado independientemente del sistema en el que se este cursando los estudios

rechazamos la lomce porque no tiene porqué regular el uso de las lenguas

es competencia exclusiva de las instituciones vascas y cualquier pretensión legislativa sobre este tema por parte de las instituciones del estado

al margen de que sea más o menos acertada supone una intromisión inaceptable y una involución inconstitucional señor oyarzabal en este caso tenía usted razón le voy a dar la razón efectivamente

a nosotros más competencias reguladoras sobre la asignatura

baita ere zuri esan que al recibir las propuestas de su grupo nos hemos quedado ojipláticos

con la lomce sinceramente pero las hemos recibido muy positivamente y votaremos a favor de algunas de ellas eso sí

coinciden casi literalmente con las propuestas efectuadas por los demás grupos durante la tramitación de la ley en las cortes contenidos que no habían sido aprobados por su partido pero bueno aun así nos alegra y como ya le he dicho votaremos a favor y también decir que
votaremos a favor de algunas de las propuestas de upyd isiltasuna mesedez pertsona bat hitz egiten ari da eta eskerrik asko

mano alzada una por una tpdas las votaciones

erdibideko zuzenketa bozkatu dugu ya hemos votado antes no la treinta y seis con la diecisiete hemos votado antes la diecisiete del psoe

no no no que me he confundido yo onartuta geratu da hamaikagarrena ebazpena